hoy estamos aquí para hablar sobre la ley vasca de servicios sociales una ley pionera una ley que nos hace estar a la cabeza y reconocer el derecho de la ciudadanía vasca a acceder a los servicios sociales

el derecho a las prestaciones y servicios sociales mediante la regulación y ordenación de un sistema vasco de carácter universal legea berez polita da profesional

buru nekagarri bihurtu da no nos malinterpreten

es una ley que merece todo nuestro respeto e incluso un aplauso por ser una ley compartida y consensuada por esta cámara por ser una ley que sobre el papel da un paso adelante en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas como algo multidimensional

en esta línea desde nuestro grupo parlamentario en elkarrekin podemos venimos defendiendo que no hay derechos de primera y de segunda

pero para eso es fundamental que nos paremos a reflexionar entendemos que hay que pensar y que en este caso no estamos aquí para ponernos medallas o para ver quién consigue más proyección mediática este debate que tenemos tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de la población y con ese respeto tenemos que abordarlo

hay cuestiones que nos preocupan y que consideramos que quedan bastante bien descritos en la proposición que abordamos pero nos parece importante

y sabemos que el despliegue del sistema vasco de servicios sociales está siendo desigual y que según donde vivas vas a encontrar una realidad y una forma de ejercer el derecho u otra porque lo dice el ararteko y comprobarlo es tan simple como preguntar también a cualquier persona usuaria

las herramientas de trabajo de los servicios sociales no son las mismas y por lo tanto el derecho no se ejerce en igualdad de condiciones y muchas veces ni existe coordinación ni comunicación ni planificación

porque también sabemos que nos queda bien de trabajo por hacer porque es fundamental abordar la normativa que falta los procedimientos que aún no existen y las desigualdades que nos señala el ararteko entre otras cosas porque la ponencia parlamentaria es un marco sosegado en el que poder abordar cuestiones de esta magnitud con una perspectiva global que beneficia a la ciudadanía y que se centre en ella

por acabar con los desajustes y las desigualdades que a día de hoy se dan en el sistema vasco de servicios sociales porque los agentes sociales conocen la realidad muchas veces mejor que las propias instituciones su participación es un elemento imprescindible permítanme

de que no será la última no estamos aquí para hacer lo que a nuestras brillantes cabezas se le ocurra estamos aquí para trabajar por la ciudadanía

con ella porque las actitudes que hemos visto hasta el momento no son de recibo no es de recibo que cuando se le pregunta por el informe del ararteko la señora consejera responda cuestionando los resultados de otra institución escudándose en que se ha hecho con datos sin actualizar nosotras se lo digo señora artolazabal tenemos un profundo respeto por este informe

particularmente nos parecen adecuadas las de carácter cualitativo contando con la opinión de profesionales y cargos públicos expertos en el sector entre las que han estado personas de mucha relevancia en el ámbito y muchos cargos públicos que ocupan o han ocupado espacio en su gobierno pero además de respeto

cuando se elaboró este informe ayuntamientos y diputaciones no tenían los deberes hechos

permítame que lo dude porque por mi actividad anterior conozco de primera mano el ámbito no nos queremos detener más en esto porque entiendo que cuando el ararteko venga a comparecer a la comisión tendremos más espacio para hablarlo pero nos parece importante señalar

porque no puede ser que la puerta de entrada al sistema de los servicios sociales carezca de información

no puede ser que el despliegue de la cartera en los municipios carezca de presupuestos suficientes o constatemos una ausencia de modelo común en el trabajo

creo que son cosas suficientes que nos dan para pensar y sobre todo para hacer de esta ponencia no solo una necesidad sino una urgencia como ya he comentado en elkarrekin podemos no creemos que haya que jugar con algo tan importante para la ciudadanía buscando sacar rédito político

y pensar soluciones integrales que puedan implementarse de una forma rápida también consideramos que hay que hacerlo entre todas

las que de un modo u otro tenemos la voluntad política de hacerlo y desde luego las que como ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo nosotras

porque requiere mucho trabajo también sabemos que hay cosas que no solo dependen de este gobierno

hoy no vale jugar a que no ha habido tiempo o no tenemos desarrolladas todas las herramientas

no de posibilidad dónde está la voluntad política de este gobierno y dónde la de los partidos que la soportan busquemos espacios para debatir y reflexionar conjuntamente

y sobre todo para cumplir la ley no podemos cerrar los ojos a la evidencia de que hay cosas que no son precisamente pocas que no se están haciendo del todo bien no es tolerable ni justo para la ciudadanía que a veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis un día después de hacerse efectivo el derecho subjetivo a los servicios sociales la diputación de araba

seguir prestando servicios de competencia municipal porque es fundamental dotar de sus funciones y presupuesto para el despliegue a los ayuntamientos

el sistema vasco de servicios sociales apuesta por el modelo comunitario y por consolidar una atención primaria que se constituye el factor clave para la calidad de vida de las personas en sus entornos deseados fortaleciendo la autonomía

esperamos sinceramente que den la oportunidad de compartir un espacio de reflexión conjunta entre el poder ejecutivo el legislativo y personas y agentes sociales con conocimiento en la materia para buscar soluciones y evitar que en cuestiones como las que he mencionado se perpetúen para desgracia de la ciudadanía vasca

hoy apoyamos la proposición de eh bildu y lamentamos profundamente el predecible rechazo del resto

el objetivo o la población afectada tienen que ser primordiales y estar en el centro de la acción de esta cámara si hoy su voto termina siendo contrario a esta proposición

por último querría mencionar que consideramos que el derecho subjetivo a los servicios sociales ha de ser una prioridad en el quehacer del gobierno

pero no el único que hay que dar si no continuamos este camino solo conseguiremos vaciar ese derecho de contenido y eso no nos va a llevar a ninguna parte a ninguna de las aquí presente pero sobre todo supondrá dejar en la estacada

muchas de ellas en una situación muy complicada me gustaría recordarles lo que decía el viceconsejero de asuntos sociales en el momento en que se trabajó esta ley fernando fantova

y para que eso sea posible en elkarrekin podemos entendemos que todas debemos poner nuestras manos y poner este tema en el lugar de relevancia que tiene eskerrik asko

en relación a la constitución de una ponencia para que pueda

que la legislación reconoce con la participación de distintas instituciones y agentes sociales como se ha dicho aquí la primera ley data de mil novecientos ochenta y dos luego vino la ley de mil novecientos noventa y seis y con el fin de adecuar la normativa vigente en esos momentos a la realidad social a los desafíos existentes en esos momentos en la comunidad autónoma del país vasco

doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre las novedades de esta ley radican fundamentalmente en varios aspectos el elemento central de esta ley es la declaración de derechos

constituidos en un derecho a la ciudadanía con el fin

ejercicio efectivo de dicho derecho se configura por tanto el sistema vasco de servicios sociales de responsabilidad pública y cobertura universal se articula un conjunto de prestaciones y servicios para dar una respuesta eficaz y eficiente como he dicho anteriormente a los desafíos presentes y futuros que tenemos como sociedad la ley como todos ustedes saben define el catálogo de prestaciones y servicios que integran el sistema vasco de servicios sociales que configuran como he dicho anteriormente

vasca así se elaboró el plan estratégico de servicios sociales

y la consolidación de un servicio vasco de servicios sociales requiere garantizar el acceso a las mismas prestaciones y servicios en el conjunto de la comunidad autónoma del país vasco

del sistema vasco de servicios sociales como un derecho universal y subjetivo cuyo cumplimiento podría hacerse efectivo a través de la reclamación ante los tribunales una vez que se ha

establecido en la que la propia ley marca para la universalización del sistema vasco de servicios sociales como ustedes saben se situó

por lo tanto de conformidad a las previsiones de esta ley se dictó el decreto

que regula la cartera de prestaciones y servicios sociales y de esta forma se establece el catálogo de prestaciones y servicios correspondientes

en el ámbito judicial que reconoce la propia legislación para hacer efectivo el ejercicio del derecho subjetivo existe la alta inspección que también está regulada

como digo esta figura se recoge en la ley en el artículo ochenta y dos que señala que al gobierno vasco le corresponde la alta inspección en materia de servicios sociales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo proclamado en el artículo dos

el informe del ararteko sobre la situación de los servicios municipales en la comunidad autónoma del país vasco señala una serie de deficiencias en el desarrollo de la ley de servicios sociales desde luego habla de información suficiente habla de un desarrollo normativo muy lento incluso

quedan aspectos concretos pendientes pero en donde se centra

que para nosotros es fundamental y por eso también hemos planteado

necesario que luego vamos a tener ocasión en esta cámara de hablar sobre esa cuestión que es la reforma y la modificación de la ley de aportaciones estamos hablando aquí

el acceso a los derechos subjetivos a los servicios y prestaciones que se garantizan en la ley de servicios sociales que se configuran estos derechos como derechos subjetivos pero está claro que una dificultad están teniendo las instituciones de que tienen que prestar estos servicios que son esencialmente

primeras administraciones o administraciones más cercanas es la falta de financiación que tienen para hacer frente a muchas de las competencias

por lo tanto señorías y señora guanche cuando hablamos en esta tribuna de plantear debates reales vamos a hablar de plantear debates reales y debates efectivos

lleva trayendo en los primeros plenos del arranque de esta legislatura iniciativas que tienen que ver con los problemas reales trajimos una propuesta para

para elaborar un plan de reforma de lanbide hemos traído hoy también una propuesta para elaborar un plan interinstitucional de empleo en el ámbito

del país vasco con la participación de las distintas instituciones y por eso posteriormente a este debate vamos a debatir la modificación de la ley de aportaciones

a las competencias que tienen encomendadas tienen ustedes una magnífica oportunidad de subsanar muchas de las deficiencias

esta tarde en este debate y votar la iniciativa del partido popular que en su punto dos dice claramente que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a consensuar en el consejo vasco de finanzas un proyecto de ley que eleve el coeficiente de participación de los ayuntamientos y diputaciones

que haga posible la financiación de los servicios sociales por lo tanto vamos a hablar de realidades en ese sentido tengo que anunciar que vamos a votar en contra de la propuesta

porque creemos que no es el momento de configurar una ponencia

el derecho está reconocido en la ley tuvimos ocasión de debatir profundamente sobre esta ley y todas las enmiendas

se recoge en la ley como una competencia propia del gobierno vasco a raíz de una enmienda original del partido popular creemos que eso desde luego no es la solución y la solución puede ser desde luego que esta cámara

la iniciativa de la elaboración de una ley de aportaciones que dote de más recursos

en el ámbito de los servicios sociales por lo tanto señora guanche señora kortajarena si hablamos de debates reales y efectivos pues tengan más en cuenta las iniciativas

para solucionar los problemas que nos traen ustedes a través de otras iniciativas a esta cámara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea

muchas gracias presidenta señorías

del derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales mi grupo parlamentario los socialistas vascos

porque no estamos de acuerdo con la necesidad de constitución de una ponencia parlamentaria en esta materia

ni en el fondo ni en la forma no estamos de acuerdo de que se plantee la ponencia con un plazo de una duración

un diagnóstico previo porque cuando se quiere hacer a lo mejor un estudio un debate amplio tranquilo sosegado como señalaban el ponerle ya una fecha de caducidad a la ponencia ya de partida nos parece ilógico pero es que además por otro lado

y creemos que le corresponde al gobierno en coordinación con el resto de instituciones el llevar a cabo ese trabajo

es tutelar la acción de gobierno podían haberlo planteado

cuando se gestó el decreto y no lo hicieron su grupo no lo hizo y además

el decreto de cartera del año dos mil quince como dieron su apoyo también a la ley municipal

nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa que hoy debatimos pero además también estamos

los socialistas vascos hemos participado activamente en el desarrollo del modelo social con el que hoy contamos en euskadi y lo vamos a seguir haciendo

el sistema vasco de servicios sociales de carácter universal bajo responsabilidad pública y el deber de coordinación y cooperación de las administraciones públicas entre sí

establece el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales a todas las personas titulares del derecho que cumplan los requisitos de acceso a los mismos

delimitar los servicios que deben ofrecer los municipios

de la ley de servicios sociales del dos mil ocho y para los socialistas el desarrollo y fortalecimiento de las políticas sociales ha sido siempre una de nuestras prioridades políticas lo fue en la anterior legislatura

legislatura hemos sido el principal defensor de las mismas ejerciendo la oposición

y acordando en positivo para conseguir fortalecer y ampliar dichas políticas públicas creemos que los servicios sociales se han de configurar

por el mero hecho de ser ciudadano en igualdad de condiciones y sin que se pueda sufrir

en el acceso al ejercicio de dicho derecho la crisis económica ha aumentado las posibilidades y causas para que los ciudadanos puedan caer en exclusión social

que aun contando con trabajo no salen de la pobreza y la pobreza infantil ha alcanzado niveles superiores a los de los adultos somos conscientes de ello por eso apostamos por una intervención pública decidida y fuerte con el fin de que se pueda garantizar por encima de todo la igualdad de acceso y oportunidades para toda la ciudadanía

de servicios sociales público y universal el desarrollo de la ley ha sido lento estoy de acuerdo y no es hasta el dos mil quince cuando se ha aprobado el decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales toca desde el gobierno vasco y el resto de instituciones diputaciones y ayuntamientos seguir dando los pasos necesarios para garantizar

sin que se produzcan desequilibrios la misma ley de servicios sociales reconoce el deber de cooperación y coordinación interadministrativa algo inherente a un sistema integrado de servicios sociales como el que nos hemos dotado en nuestra comunidad autónoma así como la aplicación del plan estratégico de servicios sociales vigente que constituye

es sobre todo una herramienta de planificación para las administraciones públicas vascas con el fin de consolidar el sistema vasco de servicios sociales y avanzar hacia su universalización

eso es lo que toca en estos momentos por todo ello consideramos que no procede la creación de la ponencia parlamentaria para la garantía del derecho
de acceso a los servicios sociales y nuestro grupo votará en contra de la iniciativa presentada nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

elkarrekin podemos izan ezik oraindik eratu gabe baitzegoen como dice la iniciativa original en mil novecientos ochenta y dos se aprobó la primera ley de servicios sociales de la cav con una visión pionera

promoviendo y garantizando el derecho de toda la ciudadanía a recibir servicios sociales habiéndose desarrollado hasta convertirse en otro de los pilares de nuestra sociedad de bienestar

y garantía del derecho a los servicios sociales se aprobó la ley doce barra dos mil ocho tal y como

portavoces que el desarrollo de dicha ley ha sido más lento del que nos hubiera gustado pero no es menos cierto que el decreto ciento ochenta y cinco barra dos mil quince de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales

todas las personas que cumplan los requisitos establecidos podrán reclamar el cumplimiento de dicho derecho el derecho subjetivo a los servicios sociales lo establece la ley y el decreto de cartera no es más que la concreción de los servicios y prestaciones a los que la ciudadanía tiene derecho

se ha materializado la universalización del sistema vasco de servicios sociales y las personas

derecho subjetivo reconocido desde el año dos mil ocho beraz berriz galdetzen dizut zergatik eta zertarako sortuko dugu legebiltzar lantalde bat

y lo que dice el ararteko en ese informe sobre los servicios sociales señora guanche es una foto de un momento fijo de un momento determinado y muy anterior en el tiempo al momento de su publicación donde muchas de las pegas y disfunciones habían sido superadas tendremos tiempo de todas formas de hablar sobre esto cuando venga el ararteko a explicar el informe podremos hacerle preguntas etcétera y también nos gustaría contar con el punto de vista de los municipios y diputaciones forales al respecto porque son parte involucrada respecto al tema de la diputación foral de álava que decía y los ayuntamientos bueno como usted

de araba pues es la que es y evidentemente la diputación está dando unos servicios porque los propios ayuntamientos no pueden dar lo importante yo creo que es que el servicio

dado y sea dado en la mejor en las mejores condiciones posibles azaldutako guztiagatik ez dugu oinarrizko ekimena babestuko eta beraz

beno a ver si no se me queda nada señora

sobre los debates profundos y sus proposiciones yo no me quiero sacar demasiadas fotos porque de hecho les tengo bastante tirria pero

preocupar o le preocupa tal vez usted no lo sepa o tal vez tengamos realidades diferentes

que tienen sus funciones pero también es verdad como me dice siempre un buen amigo que el derecho administrativo está pensado para que en colectivo uno no se pueda defender

o un posible problema que puede tener el sistema creemos que el conocimiento que se puede tener por parte de la ciudadanía sujeto de derecho al final también es un conocimiento

es intentar tener un conocimiento global del sistema ocho años después de la aprobación de la ley

no creo que el único motivo de aprobar esta ley fuese adaptarse al momento creo firmemente que era reconocer el derecho si me equivocaba pues bueno en cualquier caso la ley ya he dicho al principio de mi exposición que me gusta

su rechazo a hablar las cosas yo creía que en este parlamento veníamos a hablar

con la defensa y el orgullo que para ustedes supone esta ley históricamente me sorprende

el nivel de nervios que denota su exposición respecto a que volvamos a hablar algo que no es competencia necesariamente del parlamento aunque yo

creo que sí creo que la función de control es una competencia de este parlamento y creo que esa ponencia puede ser una manera de ejercerlo tal vez me equivoque como he dicho

señora arregi el derecho está garantizado por la ley

políticas sociales al que vienen tres asociaciones a informar sobre el cumplimiento del derecho

de verdad yo he trabajado muchos años como trabajadora social y yo conozco la normativa desde el saber cómo se ha ido aplicando a lo largo de este tiempo

entender exactamente cómo funciona y me sigue costando a día de hoy entender del todo cómo

de poder querer un espacio para dialogar que se ve que es una petición demasiado loca pero bueno yo

sobre el informe del ararteko es verdad tendremos tiempo

sacaremos mucho jugo a eso lo que yo sí creo desde la experiencia que tengo

lo queramos reconocer más o menos la realidad es distinta y también me sorprende el denotar un poquito de rechazo a la participación

en esta reflexión que vamos a tener con el ararteko a mí también me gustaría que le diéramos la oportunidad no tengo una solución mágica ni un proyecto

de escuchar a la ciudadanía usuaria a la población beneficiaria del derecho porque nunca nos detenemos a escucharla yo creo que de ellas es de quien tendríamos bastante para aprender

yo personalmente apostaba por la ponencia como una vía de diálogo porque la verdad es que espero que no nos encontremos con un montón de reclamaciones por la vía administrativa por la vía judicial del derecho subjetivo espero que no se dé esa realidad desde luego coincido

porque tal vez desde aquí las cosas se ven distintas yo todavía no me he quitado

y sí que tengo la sensación de que digan ustedes lo que digan esto es como los cuadros impresionistas que desde lejos se ven preciosos pero cuando te acercas a veces solo

esperemos poder darle forma a todo eso eskerrik asko

laguntza emateko por lo tanto reconocemos que

pero la deficiencia fundamental y el déficit fundamental

en la implantación de la cartera de servicios y prestaciones regulada en el decreto correspondiente sobre todo y teniendo en cuenta las propias conclusiones del ararteko y las propias recomendaciones vienen por la falta de financiación que tienen estas instituciones para

dar la cobertura adecuada de estos servicios y prestaciones

a costa o de poner ellos dinero dinero y quitándolo muchas veces de otras cuestiones por lo tanto sí queremos que tengamos unos servicios sociales de calidad y que se puedan garantizar los derechos objetivos como le digo

ley incluso está la posibilidad de ir a los tribunales una vez

vayamos a solucionar el problema de raíz señora guanche cuando usted me decía debates reales sí vamos a traer a esta cámara debates reales pero es que la solución a la financiación de los servicios sociales

las diputaciones y ayuntamientos que tienen que hacer un sobre esfuerzo financiero para garantizar precisamente las prestaciones y servicios que están previstos en el catálogo de prestaciones y servicios

del dos mil quince pasa por dotar económicamente de forma suficiente a estas instituciones para que pueden hacer frente a estas necesidades por eso le decía

de dar solución y una solución de raíz a la iniciativa o a los problemas que ustedes nos han planteado hoy aquí en relación a los servicios y prestaciones

pues es la ley de aportaciones tenemos luego el debate les voy a seguir atentamente el grupo eh bildu no tiene enmienda sí tiene enmienda

pero también habláis de garantizar la financiación de los servicios sociales por lo tanto la forma de garantizar los servicios sociales es que las diputaciones y ayuntamientos tengan más recursos el grupo podemos no tiene enmienda por lo tanto esperemos que voten favorablemente la iniciativa del partido popular que es la que da solución al problema que ustedes hoy nos han planteado

señora kortajarena usted ha señalado

que han presentado esta ponencia porque querían participar de consenso etcétera sin embargo ustedes han presentado esta iniciativa pero no han levantado ni un teléfono ni han mandando un correo por lo menos a

cero con lo cual cuando alguien intenta buscar un consenso lo mínimo es preguntarle a otro grupo qué es lo que piensa o qué postura va a tener

ante el tema que se plantea y su intención puede ser muy loable pero nosotros no la compartimos y he manifestado

que no estamos de acuerdo con la creación de la ponencia y le he expuesto todas las razones y le he recalcado que ustedes podían haberlo planteado cuando se gestó el decreto decreto que ustedes apoyaron y ustedes apoyaron la ley municipal y ahora

no es necesaria y tenemos nuestro derecho también de creerlo y señora guanche

que no creamos necesario la creación

no quiere decir que no nos preocupemos por el correcto desarrollo del sistema vasco de servicios sociales usted en su primera intervención ha dicho es que si no me apoyan es que no les interesa o no creen en eso

nosotros podemos no estar de acuerdo o no ver que es conveniente la creación de la ponencia y ya nos encontraremos en otras iniciativas como me encuentro

cuando considero que nos podemos encontrar con otros compañeros

de su grupo parlamentario y señora guanche nervios ninguno y rechazo al diálogo cero

pero claro si hay algo que no considero que es oportuno también

en eso que yo considero o mi grupo no considera que eso es conveniente y eso es lo que hemos hecho por eso vamos a votar en contra de la enmienda

evidentemente que estamos a favor del sistema de servicios sociales y estamos dispuestos

y a dialogar y a intentar mejorar lo que haga falta pero no vemos la necesidad de una ponencia para garantizar el derecho subjetivo porque ya está suficientemente garantizado
tanto en la ley como en la normativa de desarrollo besterik ez eskerrik asko arregi andrea

hay mucha gente que piensa que las trabajadoras del hogar son supermujeres pero

de serlo que más que eso lo que son son las esclavas del siglo veintiuno porque quién entiende que soporten las jornadas laborales que soportan
en ocasiones sin salir de la casa en la que trabajan en todo el día isiltasuna mesedez

descanso semanal con un sinfín de quehaceres que a medida que pasa el tiempo siempre van en aumento de forma impuesta y sin capacidad de negociar

dispuesta a sufrir sin posibilidad de replicas situación de desprecio maltrato etcétera y con unas condiciones laborales tan precarias que algunas veces no parecen que sean trabajadora sino siervas la legislación les protege muy poco las protege

porque de hecho no las considera trabajadoras al uso esto es un reflejo más de lo que ser mujer

laboral y legalmente el régimen especial de las trabajadoras de hogar es un régimen de especial precariedad y lo peor es que no hay intención alguna de cambiarlo son trabajadoras que por ser controladas por lanbide no hay ninguna pega pero para realizar las inspecciones de trabajo necesarias para valorar

que ellas realizan como las condiciones de trabajo de esas mujeres

se viola la privacidad en el domicilio de las empleadoras porque la dignidad y los derechos de las trabajadoras en su mayoría mujeres inmigrantes no parece importar a nadie según la epa del tercer trimestre de dos mil dieciséis trescientos catorce mil trabajadoras en el estado son empleadas de hogar

son mujeres migrantes el treinta por ciento de las personas empleadas en el sector doméstico en el estado no están afiliadas a la seguridad social según datos de la organización internacional del trabajo y hay miles de trabajadoras que por precarias

ya que cargamos sobre las más precarias la responsabilidad de pagar la seguridad social esto supone un doble problema el que afecta a lo colectivo la cotización como base de mejora colectiva de las condiciones de las personas

y el que afecta individualmente a las empleadas que al no estar regularizadas no existen ni tienen derechos como otras trabajadoras oficialmente teniendo en cuenta que solo las personas dadas de alta en la seguridad social el número de empleos de trabajo

migradas también aquí se trata de un tipo de empleo claramente feminizado precarizado e invisibilizado estos datos no son más que la punta del iceberg se estima que hay casi tantas trabajadoras del hogar en situación no regulada sin protección social como las que sí lo están de las cuales

de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y cuidado en la comunidad autónoma de euskadi en este estudio constataba que el cuarenta y dos por ciento de las mujeres migradas

y un tercio de ellas sufren condiciones de trabajo no deseadas por ninguna de nosotras

salarios indignos que provocan que muchas de ellas no puedan cubrir sus necesidades más básicas y sin querer aburrir con datos hoy las compañeras de la asociación de trabajadoras de hogar nos han presentado sus estadísticas y esos datos se pueden bajar mucho más a la realidad

el hecho de que aunque la ley de empleo prevea un máximo de sesenta horas semanales de prestación la realidad es que más del setenta y cinco por ciento de las internas

y cerca de un veinte por ciento de trabajadoras tanto internas como externas no tienen vacaciones a esto yo sus señorías

que realizan un tipo de trabajo en el ámbito de lo privado oculto y por lo tanto poco valorado

sus condiciones de trabajo son pésimas debido a la soledad el tipo de tareas y el poco respaldo institucional que reciben

muy poca capacidad para negociar sus condiciones de trabajo y una falta de conocimientos sobre sus derechos lo que les lleva a soportar horarios imposibles poca definición de sus tareas

para que queden resueltas en gran medida las necesidades de cuidado de nuestra sociedad la mayoría de las trabajadoras de hogar se dedican al cuidado de personas mayores y a pesar de tener

que algunas incluso no dispongan de las horas semanales de descanso a que tienen derecho por ley y que otras tantas no tengan ni diez horas de descanso

desde elkarrekin podemos creemos que la desprecarización de las trabajadoras y en particular

la de las mujeres que desempeñan su labor como trabajadoras de hogar es una prioridad puesto que entendemos que es indispensable el reparto de los cuidados y de los empleos

que el empleo de las personas trabajadoras de hogar debe de ser y estar en el régimen general y con la misma protección que el resto de trabajadoras y trabajadores entendemos así mismo que el invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados responde

que no se ajusta al que defendemos en elkarrekin podemos un modelo el actual que se corresponde por encima de todo con el sistema heteropatriarcal que luchamos por erradicar

que sufrimos las mujeres todos los días lo que hoy presentamos en esta cámara son una serie de reivindicaciones por parte del colectivo

que creemos que son necesarias para empezar a buscar medidas para cambiar las condiciones laborales de estas mujeres no obstante entendemos que tal vez es mejor recoger las reivindicaciones en orden y por ello

porque consideramos que es indispensable la realización en primer lugar de estudios en el plazo

que diagnostique la situación que sufren las mujeres trabajadoras de hogar en la comunidad autónoma vasca así como las necesidades que ellas se cubren teniendo en cuenta en el estudio tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora y otro estudio

para definir con la mayor claridad posible la dimensión del problema

y planteando medidas a aplicar por último y dado que es de justicia y por que así

es fundamental instar al gobierno a rectificar el convenio ciento ochenta y nueve de la organización internacional del trabajo

porque es nuestro deber reconocer a las trabajadoras en toda su dimensión y por lo tanto garantizar la adecuación de sus condiciones a las del resto de trabajadoras

ratificar este convenio supone que se les informe sobre los términos y condiciones de trabajo

supone que se las proteja contra la discriminación se les aseguren condiciones de vida decentes y que tengan acceso a los mecanismos de denuncias laborales esta es una

todo el parlamento respaldo es un primer paso que hoy la mayoría de esta cámara respalde esta proposición de ley

esto no va de sacar rédito político sino de mejorar las condiciones de vida de una parte esencial de la ciudadanía vasca esto va de respetar la dignidad de todas las personas de reconocer la enorme e incalculable importancia de los cuidados y de ponerlos en valor como

gracias señora presidenta buenas tardes a todos este es un debate

que ya se ha mantenido más veces en este parlamento se mantuvo por ejemplo en el año dos mil diez cuando se instó a realizar un estudio sobre las trabajadoras del hogar en la comunidad autónoma vasca estudio que se realizó

todos reconocíamos la discriminación a la que estaban sometidas en muchas ocasiones las personas trabajadoras y trabajadores

y que teníamos todos que actuar precisamente para acabar con estas discriminaciones para mejorar su situación laboral y su protección social y que teníamos

precisamente un diagnóstico de esa situación según ese estudio alrededor del quince por ciento de los hogares vascos tienen una empleada de hogar

que tienen personas en situación de dependencia que en muchas ocasiones también están siendo

por una persona trabajadora del hogar y así en el año dos mil trece también la asociación de trabajadoras del hogar de bizkaia expusieron esta situación cuando comparecieron en este parlamento según ese mismo estudio de hace

y había que distinguir como bien decían dos situaciones cuando el servicio se presta

en cuyo caso estaríamos ante una relación laboral ordinaria entre la empresa y la trabajadora o bien directamente en una relación laboral especial del servicio en el hogar

y con datos mucho más actuales con exactitud en qué situación se encuentran en este momento el colectivo realizar un nuevo estudio que nos diga cuántas personas

referencia se entra porque en las estadísticas de las

se puede informar de muchísimas cuestiones al respecto se recoge que se han aumentado en ocho puntos las cotizaciones a la seguridad social y que también se ha

no ha sido tal sino todo lo contrario y además hay que

está muy bien y contiene muchas estadísticas sí que es verdad que ellas están limitadas

no es posible conocer todo el colectivo en su amplitud por tanto

de elkarrekin podemos de realizar ese diagnóstico porque es un paso previo para después diseñar ese plan de acción que dé cumplida respuesta a las necesidades y las cuestiones que se han planteado en esta cámara que están planteadas o se han planteado algunos grupos políticos que vienen recogidas como digo en esa página web y las que puedan ir surgiendo a medida que se vaya haciendo ese estudio como décimos ese era también el punto uno de la enmienda que nosotros presentábamos y

la votación si es posible votarla por puntos y después explicaré

cuestiones que se han planteado y que se planteaban también en la iniciativa original y que se han planteado en las distintas comparecencias es que haya una intermediación por parte de lanbide

es verdad como dijo el consejero en ese momento

porque va de suyo porque así está recogido en la propia definición de los objetivos de lanbide sino que tiene que ser una realidad y sin querer insistir aquí en las críticas que en otras ocasiones hemos hecho a lanbide

tampoco en este aspecto y quizás menos que en ningún otro lanbide es un referente de intermediación precisamente por ello nosotros solicitábamos

y empleadoras y entre las trabajadoras y trabajadores del hogar sus respectivos derechos y obligaciones

se ha presentado de esto no se recoge nada y también pedíamos la adopción de medidas que ayudasen a aflorar la economía sumergida

formaba parte de nuestra enmienda y aparecía en el punto cuatro de una enmienda que en un primer momento se nos presentó pero que finalmente

y debieran adoptarse medidas porque según los propios datos de la asociación en algunos tramos horarios una tercera parte todavía del empleo en los hogares familiares está en economía sumergida también el colectivo

por distintas vías que a través de la inspección de trabajo se garantice el cumplimiento de las condiciones de trabajo tanto cuando se hace directamente como cuando se hace a través de una agencia de colocación y para eso sí que tenemos competencia en el gobierno vasco es el gobierno vasco el encargado de controlar el cumplimiento de las relaciones laborales precisamente el otro día

y también la representante del partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados a propósito de un debate en este tema señalaba que lo que hacía falta es una mayor actuación inspectora

del representante del partido nacionalista vasco aquí a quien le corresponde es al gobierno vasco

ha desaparecido en ese borrador aparecía pero ahora no también osalan tiene mucho que decir y mucho que hacer

del trabajo de las trabajadoras del hogar porque en el trabajo en el hogar existen riesgos de todo tipo y osalan entre sus funciones precisamente

a trabajadores y empresas por tanto puede informar tanto

en las debidas condiciones de seguridad y salud para lo cual debe de adoptar medidas eficaces también se recoge en el punto cinco de la enmienda y

al punto dos que se recoge en la enmienda de transacción nos vamos a abstener nosotros habíamos propuesto

redacción alternativa que era que nos suscribiesemos ese convenio de la oit cuando fuera posible y cuando

hay que señalar que ese convenio solo ha sido ratificado por veintidós de los ciento ochenta y cinco países

seis pertenecen a la unión europea muchas de las prescripciones contenidas en ese convenido ciento ochenta y nueve y en la recomendación doscientos uno ya están incluidas en la legislación española

cuando el conjunto de las recomendaciones suscritas todas ellas sean compatibles con nuestro ordenamiento jurídico y todas sean beneficiosas para las trabajadoras como decía habíamos solicitado cambiar ese punto por otro punto que dijera

no se ha admitido y por lo tanto en ese punto nos vamos a abstener

cuando se aprobó el convenio en junio del dos mil once la legislación española estaba por debajo de las prescripciones de ese convenio pero la ley veintisiete barra dos mil once de uno de agosto sobre actualización adecuación y modernización de la seguridad social

igualmente a partir del año dos mil diecinueve se aplicará la normativa general de seguridad social en materia de filiación alta y cotización de la seguridad social con la

se regula la relación de empleo doméstico y se recogieron muchas de las cuestiones que aparecían en el convenio con lo que la cuestión

ya que como digo muchos de los derechos contenidos en el mismo ya están reconocidos en nuestra legislación

de poner en marcha medidas precisas y muchas de ellas dependen de este gobierno del gobierno vasco para que esos derechos no se queden en papel mojado nosotros por lo tanto como digo solicitamos la votación
por puntos votaremos a favor del punto número uno número tres y nos abstendremos en el dos muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eh bildutik

y cito textualmente se habla de la mejora de las mujeres en el ámbito familiar zein emakumez hitz egiten duten zehaztea falta zitzaien

el proceso socialmente garantizado es la acumulación de capital esto inhibe una responsabilidad colectiva en el sostenimiento de la vida y más aún establece una amenaza constante sobre esta que termina resolviéndose malamente en esperas feminizadas e invisibilizadas amaia pérez orozco

de una organización de cuidados injusta que está en la base de un modelo de desarrollo insostenible en el que se valora de forma

escribir un libro o limpiar las manchas de tinta eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

señorías vamos a debatir en este punto sexto del pleno la proposición no de ley del grupo elkarrekin podemos sobre medidas de garantía de los derechos de las personas trabajadoras del hogar de la comunidad autónoma

muchos de los puntos que hoy se recogen en la enmienda transaccional que hoy se va a debatir y previsiblemente aprobar en este pleno recogen las demandas de las trabajadoras afectadas y pude

en las mesas redondas a las que mi grupo fue invitado el diecisiete y veinte de noviembre en bilbao específicamente para hablar de toda esta problemática y me congratula haber podido llegar

con el grupo eh bildu y con el grupo podemos a esta transaccional porque creo que merecía la pena durante años el trabajo doméstico y de los ciudadanos

valor al trabajo productivo y se les ha reconocido salarios más bajos y peores condiciones laborales hoy se reconoce la feminización del trabajo doméstico en este sector prestando servicios muchas veces sin contratos sin horarios y sin embargo realizan un trabajo fundamental para que pueda organizarse nuestra actual sociedad la regulación arranca de agosto de mil novecientos sesenta y cinco con el decreto que regulaba la situación laboral de las empleadas de hogar como régimen especial de la seguridad social y el cambio más importante se produjo con el real decreto mil seiscientos veinte de

que mejoraba mucho las condiciones de trabajo existente hasta la fecha y que habían estado vigentes tres décadas y con posterioridad se llevó a cabo una reforma de la misma que entró en vigor en abril de dos mil trece

que no ha resuelto la situación sino que a mi juicio la ha españa es uno de los pocos países que no ha ratificado el convenio ciento ochenta y nueve de la oit adoptado el dieciséis de junio de dos mil once junto con la resolución número doscientos uno de la oit a pesar

el grupo de turín está impulsando la ratificación del convenio para mejorar la legislación existente en el sector de empleadas de hogar

reconoce el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo y garantiza que los trabajadores y trabajadoras del hogar sean tratados en igualdad de condiciones que el resto

pero para que estas normas sean de implementación obligatoria en los distintos países los gobiernos deben ratificar el convenio y como he dicho españa todavía no lo ha hecho para posteriormente transponerlo a nuestra normativa me sorprende que el grupo no haya querido firmar la enmienda transaccional que hoy firmamos solo porque recoge

convenio al gobierno de españa después de haber transcurrido ya seis años la legislación se hace compatible modificando

y un ejemplo muy claro fue en el ámbito laboral lo que pasó con la ley de prevención de riesgos laborales nosotros teníamos una normativa muy diferente

a lo que marcaba el convenio ratificado eso se hace siempre así creo que es un clamor que demandan los trabajadores afectados aunque no tanto los empleadores

hay que diferenciar además el trabajo doméstico del trabajo de cuidadores profesionales es decir de personas dependientes

en los últimos años la iniciativa que hoy debatimos incluye importantes medidas para corregir situación y en la enmienda transaccional se señala que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a realizar un diagnóstico de la situación de las trabajadoras

tanto a los trabajadores como a las personas empleadoras y se marca un plazo de nueve meses para realizar ese diagnóstico

del estado en la necesidad de ratificar el convenio ciento ochenta y nueve de la oit y la recomendación doscientos uno sobre el trabajo

domésticos y su posterior transposición a la normativa estatal y también se recoge porque es importante

del gobierno vasco implicados en la materia un estudio que defina con la mayor claridad posible toda la dimensión del problema recopile los pasos que hasta la fecha se han venido

y plantee las medidas a aplicar y se hace referencia a que se insista al gobierno del estado porque con anterioridad

se había registrado una iniciativa también referente a la exclusión del personal doméstico de las prestaciones para acogerse a una excedencia o a una reducción de jornada por labores asistenciales y en la misma

en una enmienda transaccional una referencia a la necesidad de ratificar ese convenio ciento ochenta y nueve por eso recogía la expresión

esta iniciativa que se registró con posterioridad a la que he señalado al final en este pleno antes que ella pero como le dábamos especial valor a esta necesidad de ratificación para llegar a esa igualdad efectiva en el reconocimiento de derechos de la trabajadoras domésticas nosotros considerábamos necesario que estuviera dentro de la enmienda a la totalidad que nosotros presentamos y que viene recogida en la enmienda

que hoy firmamos le doy las gracias desde luego a todos los grupos por el esfuerzo realizado para llegar al consenso al que hoy

para los intereses de las trabajadoras afectadas y que como he dicho anteriormente recoge las demandas y reivindicaciones gran parte de las demandas y reivindicaciones que nos planteaban las trabajadoras

del sector y es también importante le doy especial importancia también al necesidad e la realización de ese diagnóstico para que nos sitúe cuál es

que recoge la enmienda transaccional que realizará osalan se puedan llegar a determinar qué medidas todo el conjunto de medidas que sean necesarias adoptar para poder avanzar en el respeto a los derechos

domésticos pero también es importante como ya ha indicado el de ratificar ese convenio ciento ochenta y nueve de la oit y la recomendación doscientos uno por eso

parlamentario quiso que se mantuviera precisamente ese punto porque creo que después de seis años ya es hora de que sea ratificado y luego una vez ratificado que se transponga a nuestra normativa

parlamentario en votar por puntos
cuando llegue el momento de la votación nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

ekonomiari egiten dioten ekarpen garrantzitsua aitortzeko ya se han comentado detalles de esta importantísima contribución que se da no solo en el ámbito material del domicilio sino en el cuidado de hijos e hijas en las personas de edad avanzada personas con diversidad funcional

a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo el objetivo

incrementar esa valoración esa visibilidad esa seguridad y salud laboral la iniciativa original tenía un texto dispositivo de diez puntos

sin ninguna duda a mi juicio el texto transado que recoge solamente tres puntos podría parecer que en aras a conseguir un acuerdo entre los cuatro grupos parlamentarios firmantes nos hayamos ido a un texto de mínimos

en este debate además de mantener el buen tono que se está manteniendo aportar en este debate el detalle de que esa

es un texto con mucho calado el que hemos firmado conocimiento de la cuestión actuaciones realizadas medidas a aplicar y la referencia importantísima al convenio de la organización internacional del trabajo conocimiento de la cuestión diagnóstico sin duda la aportación de la administración era este necesario diagnóstico es imprescindible

de ese texto también se recoge la aportación y la participación de otros agentes ya se ha comentado también

se ha valorado aquí las estadísticas de la asociación de trabajadoras del hogar sin duda un excelente trabajo como reconocimos en la comisión de empleo del

cuando nos visitaron y comparecieron las actuaciones realizadas hay un claro reconocimiento de las acciones realizadas desde el gobierno vasco se dice en la segunda parte del punto tres

efectivamente se han venido dando pasos en este avance que sin duda ha habido hay que reconocer que además de márgenes de mejora

y que no son excusas del gobierno vasco sin duda una dificultad técnica por llamarlo así sería la falta de algunas competencias en nuestra comunidad autónoma otra dificultad que no se esgrime como excusa lo que ha comentado la señora arana el respeto a la intimidad familiar efectivamente y lo podemos ver como problema en todos los ordenamientos jurídicos

vemos que hay esta dificultad también las medidas a aplicar se plantea en el punto tres a osalan que además de realizar cuestiones de diagnóstico

plantee medidas plantee medidas a aplicar una cuestión esencial

quería hacer un comentario también sobre los mandatos parlamentarios porque aparecieron en alguno de los textos

original de la señora arana y también en nuestra enmienda

bueno es una cuestión realmente no son dos mandatos parlamentarios sino es uno el más cercano la fecha más cercana a dos mil catorce es

en una propuesta de resolución en un pleno monográfico que hace referencia al mandato del dos mil once en cualquier caso son de calado

que están en vigor y se siguen persiguiendo no es nuestra intención y supongo que de ninguno de los firmantes que desaparezcan

por hacer esa mención exclusivamente donde sí me quisiese

en la referencia al convenio ciento ochenta y nueve de la organización internacional del trabajo

aportado en nuestra enmienda y también efectivamente comentado en la comparecencia de la asociación de las trabajadoras del hogar

sino la recomendación doscientos uno este detalle señora arana es

nos importa nos importa la legislación y nos importa la base sobre la que se establece

más desarrollo normativo por eso instamos al gobierno

es un convenio que desarrolla en el ámbito de las trabajadoras del hogar

que recoge los principios y derechos fundamentales en el trabajo pretende respetar y promover los principios y derechos en cuatro categorías

libertad de asociación libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva eliminación del trabajo forzoso obligatorio la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo

no hay dudas en que esto es compartido me gustaría dar dos detalles sobre el convenio en sí uno referido al artículo seis donde se recogen

de resumen de lo que es el propio convenio de desarrollo

de la declaración el artículo seis recoge la necesidad de asegurar que

como los demás trabajadores y trabajadoras condiciones de empleo equitativas y decentes

recoge el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y plantea

la seguridad y la salud en el trabajo para este colectivo señora llanos nos ha convencido con toda su argumentación jurídica

argumentación jurídica tan bien trabajada es que de facto está recogido dice el convenio entonces yo le haría una pregunta qué problema hay en ratificar este convenio por parte del estado en definitiva

de la iniciativa original pero partiendo de bases sólidas y de quizás alcance a futuro a mi juicio a juicio de nuestro grupo parlamentario un buen acuerdo de base

como ha

en que se pueda votar por puntos eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

no se puede decir más claro aunque lo único que podemos hacer es decirlo más alto para

recordar que este es un primer paso pero que luego vendrán otras iniciativas que

del pnv como del psoe nos sigan respaldando porque la señora

señora llanos ha dicho que todo esto que debatimos no es nuevo y mira que llevo poco en esta cámara y lo escucho continuamente

les demos soluciones y si les damos soluciones y son soluciones coherentes y que realmente están hechas para la ciudadanía es muy probable que no tengamos que volver a debatirlas en esta cámara

aquí este debate que las trabajadoras del hogar tengan condiciones dignas de trabajo señora llanos sigo con usted hoy le ha tocado

cuando sea posible según la legislación estatal les recuerdo que tienen ustedes capacidad de hacerlas compatibles mi pregunta es por qué no lo hacen cuáles de las recomendaciones no son recomendables para las trabajadoras

ustedes como partido que tienen la capacidad de cambiar esta normativa y reconocer un acceso normalizado que no creo que estén pidiendo nada extraordinario estas mujeres

como digo a la condición de trabajadoras según el régimen general por qué no se ponen manos a la obra

en la inacción otra cosa también ha dicho que

de la proposición no de ley le recuerdo que la ha presentado elkarrekin podemos

otra iniciativa y así lo comentamos entre las dos mejor que partidos políticos

no me molesta nada que se refiera a mí es más a mí me encanta

suele ser el autor de la iniciativa cuando se le presenta en la enmienda es el que suele hablar con los grupos enmendantes para ver si es posible llegar a un acuerdo así lo hicimos el señor becerra y yo y ya ve que anterior pleno de la semana pasada llegamos a un acuerdo y es más hubiéramos llegado a un acuerdo mucho más ambicioso del que está en esta iniciativa

porque usted en su iniciativa original lo que hace es recoger punto por punto con lo cual muchos de esos temas nosotros estamos de acuerdo las propuestas que la asociación hacía no casi todas menos

de que están excluidas de las ayudas del decreto de ayudas a la conciliación y usted ha caído y luego me referiré

en lo que quería el pse que es zumbar al gobierno de españa

su gran objetivo es desde aquí hacer oposición al gobierno de españa y por eso en su intervención

pero si uno lee y yo cuando digo que no es nuevo no lo digo porque no se pueda volver a debatir las veces que sea necesario pero precisamente se tiene que volver a debatir porque no se ha solucionado entonces se tiene que traer aquí de nuevo porque

y es verdad que muchas de las cuestiones que se han planteado en las comisiones en las que han comparecido dos veces la asociación de trabajadoras del hogar muchas no tenían nada que ver con la oit que yo ahora le voy a explicar lo que nosotros proponíamos

en este gobierno vasco que se referían a lanbide y su labor de intermediación que tiene que hacer y no hace que se referían a la inspección de trabajo de las condiciones laborales no a la de seguridad social que esa sí es del estado de las condiciones laborales

se referían a osalan a que investigue si se están cumpliendo la prevención de riesgos laborales que no se está haciendo y también es competencia nuestra y todas esas han quedado desdibujadas

lo traíamos también que es hacer un diagnóstico de la situación pero que desde luego va mucho

cuando se nos propuso una enmienda de transacción también era más ambiciosa iban algunos puntos en los que nosotros habíamos propuesto nuestra enmienda como poner medidas para que saliera la economía sumergida

para que precisamente lanbide se ocupara

actuase y sin embargo como nosotros no firmábamos la enmienda por el tema de la convención pues entonces ya se retiran que tampoco lo entiendo

eh bildu sí que incorporamos un punto que en su momento había propuesto eh bildu porque lo considerábamos conveniente que yo no firme no quiere decir que si esos puntos se consideraban

mantenido porque yo ya dije que aunque yo no firmase la enmienda en el único punto en el que me iba abstener

iba a votar que sí luego en lo que no sé si no se querían poner más obligaciones al gobierno vasco que se podían haber puesto y nosotros lo que propusimos

con el resto de países de la unión europea sobre las bases del convenio ciento ochenta y nueve de la oit con el objeto de proceder a su ratificación

de todos los implicados porque por ejemplo le diré en el ámbito personal de aplicación

sino que es una persona jurídica como un ayuntamiento una empresa de trabajo temporal u otra entidad que en ese caso lo que se aplica es una relación normal una relación

si se ratifica el convenio desde luego esto está excluido por no decir la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales que como se ha dicho aquí

eso lo dijo el señor aburto en una de sus comparecencias de respuesta a ello y ya

aquí si uno después lee la transcripción de las intervenciones de la señora sánchez y menos del señor

parece que todo que en cuanto se ratifique el convenio todo va a venir de suyo y lo que no dice es que aquí

hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cuestiones demandadas asociación de trabajadores y por las propias trabajadoras del hogar y de lo que se trata es de no hacer aquí oposición al gobierno de madrid de no estar todo el día diciendo que la culpa de todo la tiene el gobierno que ya vemos que también se han unido ustedes a esa actitud quejumbrosa mantenida por el partido nacionalista vasco en la anterior legislatura y que aquí hay muchas cosas que hacer y entre otras ya se lo han dicho

exclusivamente del gobierno vasco supresión de la exclusión de las trabajadoras del hogar de las prestaciones por excedencia y reducción de jornada para cuidado y simplificación de los trámites de solicitud eso

llanos indicarle que el punto tercero referente a la inspección de trabajo

enmienda que planteamos junto con el partido nacionalista vasco a petición de podemos pero es que

tampoco veíamos mayor problema en que se quitara y eso no quiere decir que eso impida que se haga nada sino que además si se lee en ese punto tercero indicaba que la inspección de trabajo continúe con su actividad de control

de acuerdo con los mandatos parlamentarios dos mil once y dos mil catorce y es que se está haciendo y como se está haciendo se va a seguir haciendo

porque ese punto se quitara y además estaba interrelacionado y también sale

iniciativa que en mi primera intervención también interrelacionada con las empleadas de hogar estaba ese tema con lo cual tampoco había mayor problema en no recogerlo en la enmienda transaccional firmada

yo creo que realizar ese diagnóstico de situación en nueve meses

y que luego desde osalan en colaboración con los departamentos que sean necesarios se elabore

se repase y se recopile todos los pasos que se han dado por todas las instituciones y se recoja todo el conjunto de medidas que se consideren necesarias a adoptar donde puede haber medidas de información medidas de formación etcétera prevención de riesgos etcétera va a ser

todas las medidas que se consideren necesarias con lo cual aunque no se recogiera la referencia

a la aportación en su enmienda yo estoy segura que sí que se tendrá en cuenta en ese estudio global de todas las medidas que se valorará necesarias precisamente para conseguir los mejores resultados y señora llanos aquí no se trata de pedir la ratificación después de seis años que no estoy de hablando de seis meses estoy hablando de seis años que ya se aprobó

el convenio ciento ochenta y nueve decir que lo único que se quiere

pues hombre creo que no que se cae por sí mismo hombre

al partido popular pero si el partido popular sigue gobernando en españa es al gobierno de españa al que le corresponde ratificarlo

se lo tendremos que seguir pidiendo a usted y no se trata de ninguna intención de zumbar a nadie y le sorprende porque además usted suele hacer mucha referencia muchas veces al señor zapatero y se acuerda del señor zapatero y ya no está ni en el gobierno porque gobiernan ustedes y está todo el día la culpa la tiene zapatero de esto y de lo otro

no se le pueda decir a ustedes es que se les pide que ratifiquen hombre a quién se lo vamos a pedir pues lógicamente al gobierno al que está

de españa y por tanto yo creo que eso está claro y luego usted ha tenido un error en su exposición ha hecho referencia cuando los empleadores son ayuntamientos hombre si estamos hablando de trabajadores domésticos y el empleador es un ayuntamiento no estamos hablando de trabajadores domésticos estamos hablando de otra cosa en este caso pues no estaríamos

estaríamos hablando de un trabajador del régimen general pero ya no de un trabajador doméstico y bueno

por la enmienda transaccional que vamos a firmar esta tarde porque yo creo que es importante para conseguir esa igualdad que ya se recoge en el convenio ciento ochenta y nueve hace

que se recoja también dentro de nuestra normativa vigente nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea amaitzeko aiartza jauna zurea da hitza

comentar tres precisiones el hecho de que un acuerdo sea de base no significa que no sea un acuerdo ambicioso

una base sólida y quizá sea un planteamiento mucho más acertado que otros planteamientos que hemos hecho en esta misma cámara en otros momentos

una segunda precisión relacionada con los objetivos señora llanos le puedo asegurar que mi objetivo en este debate

al gobierno del estado y tampoco y tampoco es aprovechar este momento para tener

nuestro objetivo en este debate es incrementar la valoración y la dignidad de estas trabajadoras su visibilidad y su seguridad y salud laborales y en tercer lugar

para una pregunta que le hago yo a usted que siempre es usted la que hace las preguntas

que lo sea y vamos a hablar de la ley de aportaciones señor lehendakari ley

seis años de prórroga diez desde su aprobación

que se oponían a ella porque salían perjudicadas según ellas me acuerdo cómo se arregló el tema con uno con un parche

que estaban y que estamos había tres grupos que coincidíamos en lo mismo que era el partido socialista nosotros y la izquierda abertzale que no recuerdo

otra cosa distinta es lo que luego votó cada uno y digo que coincidíamos en una cosa luego otros

tenían sus discrepancias por otros motivos pero coincidíamos todos en una cosa

que es que por ejemplo en gipuzkoa en aquella época en los últimos cuatro años

y sin embargo las diputaciones y los ayuntamientos pues no habían tenido más ingresos bueno desde esos diez años aquí pues han pasado algunas cosas se aprobó una ley de dependencia la cartera de servicios sociales la ley municipal de euskadi

parte de la responsabilidad en las ayudas de emergencia social y todo esto

un incremento de gasto social de ayuntamientos y diputaciones y todo este mayor gasto social y todos estos mayores derechos que hace dos puntos en este mismo pleno hoy la tarde

de financiar ese gasto social que todos los ayuntamientos y que hasta el ararteko decía que había que financiarlo pues aquí tenemos todos los grupos

que es incrementar el porcentaje que diputaciones y ayuntamientos deben recibir de los ingresos fiscales derivado del concierto económico cosa que planteábamos algunos diez años y que no se ha hecho y no se ha hecho perjudicando exclusivamente a diputaciones y a ayuntamientos

muchas excusas para el retraso de esta ley excusas desde la legislatura pasada primero que es que había que arreglar el cupo cosa que no tenía que ver

luego que es que las diputaciones forales tenían distintos gobiernos y el gobierno vasco era otro

al parecer nadie lo intentó y en ese caso la responsabilidad corresponde a otros ahora todos son de los mismos

y resulta que tampoco se ponen de acuerdo y a lo mejor no se ponen de acuerdo porque sigue ocurriendo con esta ley lo mismo que ocurría hace diez años que es que hay dos diputaciones que salen perjudicadas o pueden salir perjudicadas y siempre sale beneficiado el mismo que es el gobierno vasco

el sistema que planteaba la ley es que diputaciones que tenían más ingresos a lo mejor se quedaban con menos dinero pero el gobierno vasco sí incrementaba sus ingresos eso era lo que pasaba y se cambió el fondo de solidaridad porque no llegaba

porque era para corregir los desfases de la propia ley y se le llamó fondo de ajuste y se incrementó hasta el uno por ciento porque así se pensaba

no lo ha hecho y pese a las excusas que se nos dice no es que la culpa es de la ley municipal la ley municipal

vasco de finanzas para dar su opinión sobre esa ley de aportaciones que evidentemente afecta mucho a la financiación de los ayuntamientos

que las diputaciones se queden con el treinta por ciento de la recaudación que es la que tienen que repartir con los ayuntamientos a que tengan un treinta y cinco porque entonces los ayuntamientos tendrán más financiación y las diputaciones tendrán más financiación

se disminuye del cupo y no pasa nada y el gobierno vasco no le pasa nada ahora decisiones del gobierno vasco

incrementan los gastos de ayuntamientos y diputaciones sin acompañar la financiación

porque esta ley es la que garantiza esos servicios sociales que hace

pero la forma de que haya más financiación es incrementar el porcentaje que corresponde a diputaciones y ayuntamientos en esa ley de aportaciones y esto lo sabemos todos cuando hablamos de las políticas activas de empleo y de lanbide

que el partido nacionalista vasco interfirió en la negociación del gobierno vasco y consiguió arrancar una competencia porque el fuero era más importante que el huevo

esa gran aportación porque es más importante como se nos dijo aquí el fuero que el huevo

planteamos tres cosas muy simples en esta proposición no de ley primero el gobierno que nos traiga ya el proyecto de ley segundo

que la distribución de ingresos por tributos concertados haga posible la financiación de los servicios sociales incrementando el de diputaciones y ayuntamientos y tercero que se corrijan los desfases que produce entra las distintas administraciones es tan simple como eso ya sé que nos van a votar en contra y ya sé que no lo van a hacer como no lo hicieron hace muchos años hombre esto también tiene otra solución porque visto

neocentralizador que se ha producido hoy en el congreso se los diputados

y en servicios sociales va a estar en el congreso de los diputados en leyes que se aprueben allí pues a lo mejor conseguimos de esa forma financiar los servicios sociales sin tocar nada de la participación de ayuntamientos y diputaciones en el actual reparto de los ingresos fiscales que tenemos

aldiro agertzen dela legebiltzar honetan nadie nadie pone en duda que es necesaria una nueva ley de aportaciones una ley equilibrada más ahora

de la ley de entidades locales necesitamos una ley con perspectiva de país ya que se trata de una ley esencial para la implementación

he sabido que esta ley determina cómo se distribuye entre los distintos niveles institucionales y entre los distintos territorios históricos de los recursos disponibles y determina también en definitiva de qué recursos dispone cada institución para financiar las competencias que tiene atribuidas por ello

alejada de visiones parciales de cada nivel institucional de hecho cada nivel institucional podría argumentar a favor de un aumento de sus recursos por poner un ejemplo

podría ser alegado por el gobierno en materia de sanidad o por las diputaciones en relación al bienestar social ambos como argumento a favor de mayores necesidades

las diferentes negociaciones de las leyes de aportaciones

en coyunturas económicas favorables y aun así no han sido siempre sencillas como ya ha explicado el señor damborenea porque

no lo serán más por la creciente necesidad de recursos para todos los niveles institucionales pero esa necesidad de recursos no se soluciona pidiendo un trozo más grande de tarta

la tarta es como es y no da más esa necesidad de recursos se deben solucionar con políticas fiscales que incrementen la recaudación con gestiones eficientes y responsables poniendo en valor el esfuerzo fiscal

de manera que la tarta a repartir sea mayor y eso no quita que la manera de repartir pueda ser más eficiente faltaría más baina ezin daitekeena izan

ironikoa da niretzat porque es contradictorio que un partido que pretende hacer posible la financiación de los servicios sociales aquí como pone en su proposición recorta el nivel del estado más de seiscientos millónes necesarios para

la dependencia es irónico que el partido popular en la parte expositiva diga de forma aséptica que desde el dos mil seis ha cambiado sustancialmente la situación económica y que nuevas obligaciones legales condicionan la situación económica de las instituciones

manifiesta es manifiesta porque las nuevas leyes en las que podríamos encuadrar la ley de estabilidad presupuestaria entre otras son leyes hechas por el propio partido popular y es manifiesta porque las políticas del partido popular han tenido un papel principal en esta crisis económica y sus perniciosos efectos en la sociedad beraz

arratsalde on guztioi último punto del orden del día y nos toca la ley de aportaciones bueno nos pilla cansados pero yo creo que el debate tiene que ser

más que nada por el procedimiento de aprobación y tendrá que discutir este parlamento sobre la ley de aportaciones pero no igual no antes de que se acuerde el consejo vasco de finanzas la ley de aportaciones es lógicamente la que establece y lo han dicho todos los que la que determina la aportación de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco

se ha de instrumentar esta tramitación lo recoge la ley de territorios históricos y dice que será

y una vez ella lo haya aprobado el gobierno elevará al parlamento el proyecto de ley que incorporará dicha metodología que previamente tiene que ser ya acordada es decir a este parlamento va a llegar sí o sí pero cuando tenga que llegar

el acuerdo en el consejo vasco de finanzas y tal como

dice que la anterior ley la de dos mil siete que aprobó la metodología para el periodo dos mil siete dos mil once que previamente y lo olvidan intencionadamente había sido acordada por el consejo vasco de finanzas y no impulsada ni ordenada por este parlamento

aprobar compartimos parte de lo que se ha dicho por otros grupos y es verdad

esencial para la implementación de las políticas públicas de la comunidad autónoma del país vasco tanto en el gobierno vasco como en las diputaciones

entre los distintos niveles institucionales entre los distintos territorios históricos y ahora también entre los ayuntamientos verdad el grueso de los recursos que tenemos y determina también de cuánto dispone cada uno para financiar las competencias que tiene atribuidas es una ley que va a definir o que define la financiación del modelo de país que queremos y en el que se debe de garantizar

los servicios públicos no solo de los servicios sociales son importantes

también es el turismo la promoción económica todos no solo los servicios sociales y ahí es donde creo que hierran

como la de eh bildu porque la de eh bildu sí que nos hace el recorrido de cómo debe de aprobarse la ley de aportaciones previo acuerdo en el consejo vasco de finanzas

que se garantice la financiación de los servicios sociales hombre de esos me imagino y de todos no creo que nos estén diciendo que unos por encima de otros los socialistas vascos

damborenea y seguimos coincidiendo en que es necesario realizar la modificación de la ley de aportaciones y se hará verdad porque nosotros queremos actualizar todas las instituciones y no es la primera vez me lo escucha decir

pero ello también tiene que por ello también compartimos con usted la necesidad de actualizar esta ley de actualizar la metodología por la cual calculamos el reparto de recursos entre la comunidad los territorios y los ayuntamientos

desde el análisis de los datos técnicos de la evolución y del resultado efectivo

y es garantizar una financiación suficiente adecuada y solidaria

de la educación de los servicios sociales de la seguridad de la vivienda del empleo de todos aquellos que se les ocurra prestan

los servicios sociales por muy importante que también sea

una ley de instituciones locales que incorpora la disposición transitoria primera que como es cortita se la voy a leer literal

dice a fin de garantizar que las entidades locales de la comunidad autónoma de euskadi cuentan con una financiación adecuada eso que a usted le preocupa tanto

y a través del consejo vasco de finanzas públicas se realizará un análisis general

para asegurar la distribución adecuada del gasto público en la administración vasca las conclusiones del citado análisis serán tenidas en cuenta en la revisión de la ley que define la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi

ya nos han mencionado el consejero que está en este momento en proceso de elaboración según las últimas manifestaciones públicas que hemos podido escuchar

y tendremos tiempo después de que lo conozcamos después de que se pueda analizar por parte del consejo vasco de finanzas cuando sea en ese momento llegar a un acuerdo entre los territorios y las instituciones y el gobierno vasco para llegar a una nueva ley de aportaciones pero no antes

el momento en el que tenemos que debatir en este parlamento y no voy a entrar al fondo de cuestiones que usted me ha planteado porque podríamos hablar de cosas que se han ido tratando durante el periodo de aplicación de la ley de aportaciones como cuáles son los efectos por ejemplo de la desarmonización

bost urtez indarrean egoteko egin zen lege bat jarraitzen du decía que hoy ya en el último punto del orden del día venimos a hablar de la renovación de la ley de aportaciones del país vasco y que en elkarrekin podemos somos de la firme convicción de que

estamos regulando las aportaciones entre las distintas administraciones vascas en base a una ley aprobada en dos mil seis y pensada

y sin embargo han pasado otros cinco años más de los previstos y en ese tiempo las realidades de nuestro territorio histórico han cambiado

mucho haciendo imprescindible hoy en día su revisión sin embargo al mismo tiempo opinamos que no solo debiera revisarse cómo se reparte la tarta entre las distintas administraciones sino el tamaño de la tarta que tenemos a repartir

tratando de no obviar en ningún momento la importancia de ninguna de las dos cuestiones a la hora de hablar sobre la ley de aportaciones

a todas las administraciones pues les cuesta hacer un mayor esfuerzo

cubrir sus necesidades presentes y que todas las administraciones reclaman por ello pues mayores recursos sin embargo la extensión de algunos derechos sociales y el despliegue de la cartera de servicios sociales como ya se ha dicho representan nuevos retos para las diputaciones

y este reto lo están teniendo que afrontar sin contar con los recursos adecuados lo que hace que sean mayores las necesidades presupuestarias de estas instituciones en nuestra opinión a raíz de estas nuevas obligaciones

actualizados de forma que toda administración pueda prestar los servicios sociales que su ciudadanía merece es necesario que diputaciones y ayuntamientos cuenten con un coeficiente de participación suficiente

a esas necesidades presentes que citábamos anteriormente en cuanto

opinamos que necesitan una revisión así como también la necesita el fondo general de ajuste ya que no cabe duda de que no está bien diseñado si observamos lo sucedido durante el último año por poner solo un ejemplo habría que plantear bien

pues efectivamente sea cumplido no podemos permitir que los territorios no tengan recursos suficientes para afrontar sus políticas

tiene como consecuencia que una vez más sean las personas más vulnerables las mayores perjudicadas de una gestión política algo

como decía antes igual o más importante aún que la distribución del pastel es el pastel en sí mismo

el fin último de lo que debemos abordar es si el conjunto de las administraciones públicas vascas cuentan con los ingresos suficientes

al gasto que la sociedad demanda y necesita porque hemos visto como durante los últimos años con la excusa de la crisis

política de reducción del gasto público particularmente en asuntos claves para el bienestar de la ciudadanía vemos por ejemplo

desde el inicio de la crisis como los recortes lejos de revertirse siguen en aumento o como por ejemplo

el gasto en educación también ha sido menor en dos mil dieciséis que aquel del año dos mil nueve y para nosotros y nosotras aquí reside

o en las distintas comparecencias de los consejeros y las consejeras el problema reside en el tamaño de la tarta a repartir algo estamos haciendo mal como sociedad cuando el dinero que se recauda

que somos nuevos que somos nuevas que tendríamos que saber que las competencias para ello residen mayormente en las haciendas forales pero repetimos una vez más a las señoras y a los señores del pnv y del partido socialista que no pueden olvidar que ustedes tienen la llave para realizar otra política fiscal

y también lo dije en el pasado pleno del veintidós de diciembre cuando por culpa pues otra vez de las erróneas previsiones

aprobando un aumento en el techo de gasto en vez de debatir sobre un suelo de ingresos

podamos ver que sus diputados generales han decidido estudiar cómo incrementar la recaudación incrementando la presión fiscal a aquellas personas que más tienen por ejemplo metiendo mano en las desgravaciones del impuesto de sociedades

progresivización del irpf porque sabemos que a ustedes les gusta sacar pecho diciendo que nos acercamos a ciertos parámetros en europa como ha pasado últimamente pero mientras por ejemplo en gran bretaña

querría dejar claro que somos firmes defensores de la necesidad de renovar la ley

pero nunca pasaremos por alto que lo que está en la base de la insostenibilidad financiera en nuestras instituciones es su actual política fiscal

a las necesidades presentes de la ciudadanía vasca y ello pasa como decía al comienzo de mi intervención no solo por cómo repartimos la tarta sino también por el tamaño de la misma eskerrik asko

siempre sale beneficiado una parte siempre sale beneficiado el mismo que es el gobierno vasco eta nik uste dut

en cuánto cifra el departamento los desequilibrios territoriales referidos

no es posible establecer un porcentaje o cuantía fija de estos desequilibrios puesto que dependen de muchas variables cambiantes en cada momento depende de la recaudación propia de la recaudación de otros territorios del resultado del fondo de ajuste y del momento temporal del momento socioeconómico que se considere eta bat gatoz

que el coeficiente de ayudas para la financiación municipal de políticas sociales

el setenta por ciento que se fijó en su día la ley de aportaciones

fue aleatorio no respondía a ninguna realidad de gasto y no lo digo yo que también

esto ya lo decía hace diez años en esta tribuna el señor

tenemos los impuestos más altos que hace diez años recaudamos menos que hace diez años luego conclusión

claro y usted sabe como yo sé que el problema de la recaudación

y que cotice más gente y que las empresas gasten más dinero

evidentemente paguen más impuestos así se recauda más y me habla del recorte de la ley de dependencia pero es que yo

de reconocidos independentistas de competencias exclusivas pero de quién es la competencia en dependencia en materia de bienestar social en derecho sociales en la carta social no es nuestra no tenemos la competencia exclusiva

o estamos de pedigüeños nos creemos el concierto económico y el sistema o de qué estamos hablando

financiamos con nuestros impuestos o a lo mejor este efecto neocentralizador de esta tarde en madrid diciendo que algunos que vamos a exportar al resto de españa el sistema vasco de salario mínimo

sí que defendemos nuestras competencias y que nosotros nos las pagamos

nadie más y bueno conflicto entre territorios

los que hacen normas que hacen disfunciones y no igualitarios a los territorios señora castelo

y cuándo toca debatir seis años de retraso

y esto también va para usted seis años de retraso es que no toca

pues estaremos en plazo y nos dice

para aprobar una ley de aportaciones ya lo conozco incluso sé

sin capacidad de enmiendas de los grupos y por lo tanto si yo quiero traer este debate aquí que por cierto es una de las competencias de este parlamento o de esta cámara y quiero decirle al gobierno en fin nos gustaría ya que de una vez

se rebajara el porcentaje del gobierno para incrementar el de ayuntamientos y diputaciones o lo digo ahora o luego no vale o lo digo antes de que venga el proyecto de ley o luego es de lectura única

porque ustedes hicieron las mismas alegaciones a la anterior hace diez años o muy parecidas a las nuestras y algunas coincidentes con esos señores

pero ustedes en vez de votar en contra votaron a favor porque es que el señor zapatero necesitaba los votos de estos señores que yo también me acuerdo

y la nueva excusa ahora es que ahora necesitamos un informe un informe que hay que hacer de las competencias que tenemos y no tenemos y me habla usted de sanidad de educación cuando se transfirió la sanidad la educación todo eso se descontó del cupo todo eso estaba valorado aquí qué es lo que no se ha valorado nunca la carta de derechos sociales

cuánto debería de costar a los ayuntamientos y a las diputaciones o las ayudas de emergencia social que ahora con la ley municipal también

como pasó con las políticas activas de empleo qué desfase ha producido la transferencia de las políticas activas de empleo y de lanbide ninguno

ninguno ninguno y nos dice mire la excusa esta del informe yo creo que

vale ya es decir todos sabemos que el diecisiete de diciembre no hubo acuerdo

las diputaciones forales y el gobierno vasco que habían quedado para ponerse de acuerdo y no se pusieron de acuerdo una vez más y ahora son todos del mismo partido y los mismos gobiernos gobiernan los dos y el análisis este que nos están diciendo que hay que hacer ahora lo hicimos hace diez años

del gasto social que se estaba incrementando en ayuntamientos y que luego este gobierno lo ha incrementado más con sus decisiones

lo hicimos hace diez años ese análisis y cuál era el problema y cómo se resolvía que también era bastante

y no me diga que la renta de garantía de ingresos sube y por lo tanto el gobierno tiene más gasto porque eso es una decisión del gobierno y de esta cámara porque usted lo puede bajar pero los ayuntamientos y las diputaciones no se lo pueden bajar y no se lo pueden quitar

sí tiene capacidad de decidir cuánto me gasto y los demás no y nosotros estamos defendiendo
que los ayuntamientos y las diputaciones tengan la financiación suficiente eskerrik asko damborenea jauna

yo algunas veces tengo dudas de si la traducción igual no llega como tiene que llegar pero en este caso no ha sido la traducción ha sido su subconsciente porque yo he dicho

con políticas fiscales que incrementen la recaudación

otra cosa es lo que usted tiene en su subconsciente que es lo que usted quería escuchar aquí pero esto ha sido lo que yo he dicho señor damborenea

me habla usted de que usted hace una defensa de las competencias de este territorio de la comunidad autónoma del concierto económico del cupo

sabe usted que yo voy a defender en todo momento pero usted sabe también como yo que desde que el cupo se negoció la última vez y la ley de cupo está en vigor la ley de dependencia es posterior por lo tanto no me diga usted que

me dice que nadie tiene que pagar nuestros gastos de si yo no digo que lo pago el gobierno de españa yo no he dicho eso en ningún momento

que me resultaba contradictorio que ustedes vinieran aquí como adalides y defensores de los servicios sociales y de las políticas sociales cuando son sus compañeros de madrid los que hacen recortes de más de seiscientos millónes en la ley de dependencia que no es lo mismo que usted ha dicho es que parecía que usted quería otro discurso por mi parte pero lo siento señor damborenea le ha salido el tiro por la culata y señora castelo

jakina gobernua sostengatzen duzuen alderdiak zarete que no es momento de debatir yo creo que debatir nunca está de más

desde que eh bildu hemos dicho que

los servicios sociales insisto el proyecto de ley se garantizará entre otros extremos entre otros extremos una financiación adecuada y suficiente del sistema vasco de servicios sociales entre otros extremos nosotros tenemos claro que hay

la sanidad la educación las carreteras de las diputaciones etcétera etcétera pero hicimos mención a los servicios sociales porque en la propuesta original del partido popular se hacía una y otra vez mención a los servicios sociales y creíamos

esa mención en nuestra enmienda pero insisto entre otros extremos y otra vez

se escuden en que es verdad y yo lo he dicho que será el consejo vasco de finanzas el que acuerde insisto

sobre esta ley que es tan fundamental pero tampoco creo que pase nada porque en el parlamento

sobre la ley de aportaciones que tan importante es para los presupuestos

por este parlamento por lo tanto poquito más que decir señor bollain bueno pues la tarta nos la repartiremos entre usted y yo

porque no les interesa porque no les interesa y cuando el partido popular insiste en poner a los ayuntamientos y las diputaciones ahí sí que

intervención es por una cuestión de política del partido popular que lo hace en esto y lo ha hecho en otras cuestiones

poner ahí la fuerza y debilitar a las instituciones comunes para debilitar todo aquello que pueda ir en camino de nuestra soberanía a posteriori

ya acabamos yo sí voy a dejar ese tiempo presidenta andrea eskerrik asko

me ha hecho usted salir señor damborenea no pensaba bajar hasta el estrado en la segunda intervención pero claro viene aquí dice algo

antes de bajar a hablar de la ley de aportaciones y cuando usted me ha dicho que esto salió de la nada pues no

en el año la ley siete barra ochenta y cinco para el trienio ochenta y seis ochenta y ocho

en función de los presupuestos generales que tenían en aquel momento gobierno vasco y diputaciones forales conforme

a partir de ahí desde la aprobación de la lth se han ido produciendo modificaciones con esos porcentajes actuales en función de los trasvases de funciones y competencias

no se hacen por nada yo creo que compartimos todos la necesidad de modificación de esta ley desde la tranquilidad y no desde la urgencia mediática y que el señor lehendakari sabe perfectamente lo que el partido popular piensa de la ley de aportaciones y del desequilibrio territorial de un territorio en concreto frente a los otros dos

me he encontrado yo al diputado general de álava del partido popular que por cierto

porque esto consiste un poco de solidaridad entre los territorios para financiar los servicios que prestamos todos los que presta el gobierno vasco los que prestan las diputaciones y los que prestan los ayuntamientos pues claro aquí ahora está muy bien hacer de los ayuntamientos pero luego cuando las diputaciones reparten su dinero hacia los ayuntamientos

pues como que son un poquito más estrechas aquí usted generosidad y allá abajo igual es menos porque el debate de municipios lo hemos tenido

excusa sería si este parlamento no hubiera aprobado que se hiciera esa ley yo no estaba aquí cuando esa ley de se aprobó usted creo que sí y usted sabrá qué salió y cuando las leyes salen usted que será de los como yo que piensan que hay que cumplirlas

en el plazo de un año estamos en ello y después de eso modificaremos la ley conociendo

y a partir de ahí tendremos que establecer cómo aportamos todo

que hagamos una cosa que no podemos hacer lo que usted quiere que allí se defienda

y la policía y la seguridad y el empleo me puedo poner así todo lo que me queda de tiempo

dígame cómo hay que modificar el coeficiente vertical que también me ha dicho el compañero de

pues yo creo que si ese fuera el acuerdo a adoptar lo teníamos ya no

claro ahora usted me defina suficiente y defíname la modificación del coeficiente

solidaridad interterritorial que se tiene que producir para que podamos entre todos pagar

me da la sensación de que usted se quejaba en que el gasto en sanidad ha bajado en la rgi en educación y que ustedes serían

gasto se mantuviera o incluso creciera y para eso verdad pues hay que tener recursos suficientes y en este caso la institución común del gobierno vasco que es el que presta esos servicios que usted mencionar y claro a eso le afecta el coeficiente vertical

no es un discurso tan sencillo es decir tengamos la tranquilidad tengamos los datos porque yo también tengo lo que son datos técnicos de otro tipo de cuestiones que afectan a la ley de aportaciones y que por

de cuáles son las consecuencias de la desarmonización tributaria entre territorios cuando a uno le da por hacer una cosa verdad porque hay una campaña electoral de por medio y ellos allí son más que nadie

tiene que hacerse en solidaridad del resto de los territorios o qué pasa con las condiciones de aplicación del fondo de ajuste o cómo se determina su funcionamiento y dotación

que se tenían que realizar o cómo ha afectado el marco europeo claro si cuestiones para tratar en la modificación de la ley de aportaciones

no solamente no es un tema de bájese el coeficiente vertical dese menos dinero al gobierno vasco y más a las diputaciones eso es un discurso muy simplista que sabe usted que lo hacen

yo soy muy joven pero por suerte hice la carrera cuando todavía el gasto en educación nos permitía hacer carreras y sé lo que es el coeficiente intelectual cuando quieras quedamos y hablamos sobre ello señor damborenea

ha dicho usted que el problema de la recaudación no viene de subir impuestos sino de trabajar más o de crear empleo bueno es un método pero

o en mi intervención yo no me refería a ello sino que quería decir que lo que nosotros no queremos es subir los impuestos o no queremos

a los y a las trabajadoras con un contrato temporal que están ganando cuatrocientos euros nosotros lo que pedimos es que exista o se realice una política fiscal que sea realmente progresiva con una mayor presión fiscal en aquellas personas que más tienen no en los que menos tienen

me da pena no poder llegar a un consenso entre los distintos

pero pues como decía espero tener una ley de aportaciones lo antes posible ya que llevamos cinco años con una ley prorrogada y

décimos que ustedes y nosotros queremos que la tarta se amplíe pero sí parece que esta cámara hay partidos que prefieren que la tarta sea pequeña

cuesta menos y aunque nos toque menos para repartir el dinero del que no necesita tarta

el parlamento denuncia sin paliativos los ataques contra la campaña puesta en marcha por chrysallis honen aurrean